esto es deshacerse del paraguas en medio de una tormenta porque tú no te estás mojando y lo que nos está pasando el debate que hemos traído hoy me parece que tiene mucho de esto que es deshacernos del paraguas

está jarreando está jarreando patriarcado por los cuatro costados y el problema en que ya el paraguas que teníamos

y que por ejemplo con la jarreada de hoy sabemos que un paraguas pequeñito no sirve para nada porque nos mojamos por los cuatro costados porque el patriarcado viene

como una buena jarreada y el problema es que nos hemos

transversalidad ya estaba en nuestras instituciones

elizondok idazten dute que era

administración vasca era el único instituto de igualdad autonómico con adscripción a la presidencia

esta era una cuestión admirada y valorada y la literatura especializada en políticas públicas de igualdad así lo atestiguaban la

con rango de viceconsejería con la presidencia del lehendakari tanto de su consejo de dirección como de la comisión interdepartamental

en el conjunto de la administración vasca hay de igualdad encargadas de la aplicación concreta de la ley vasca de igualdad en las materias que le corresponden a cada departamento y en manos de emakunde quedaba la coordinación e impulso de la actuación del gobierno en su conjunto

es relevante a la hora de valorar su capacidad de incidencia en la aplicación

no parece ser este precisamente el mejor momento este que nos está jarreando aparte de patriarcado covid mucho covid no parece ser este momento precisamente el mejor para limitar la acción del organismo que en euskadi lleva treinta y dos años definiendo y promoviendo las políticas públicas de igualdad

o departamento en eso estamos de acuerdo deben estar en la base y fundamentación de cualquier política pública porque cualquier decisión política tiene impacto en la vida de las personas e impacta asimismo en la promoción de la igualdad

egoteko la iniciativa que hoy debatimos trae como causa que emakunde se adscriba al departamento

dirige la señora artolazabal desde la coalición del partido popular ciudadanos abogamos sin duda por fortalecer las políticas de igualdad y adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para acabar con las discriminaciones

emakumeok jasaten ditugun desberdintasunak gainditzeko nos preocupa por tanto el contenido de esas políticas

en marcha para la consecución de una igualdad real y efectiva y en consecuencia que dichas políticas sean efectivas

lortzea diseñar programas de apoyo a las víctimas de violencia de género en ámbitos concretos como son la prevención la sensibilización la atención y la protección

mejorar y revisar los protocolos con el objeto de proporcionar una atención más rápida y eficaz indarrean dauden protokoloak berrikusi

eta era batean atentzio integrala emateko por lo tanto

y por que las políticas de igualdad tengan un enfoque absolutamente transversal

causa y no vamos a hacer por lo tanto una crítica al gobierno vasco por el cambio de ubicación de emakunde

de políticas de igualdad de igualdad políticas sociales y justicia puesto que también dicho departamento engloba como su nombre dice

creemos en un tratamiento de estas acciones de manera transversal y no queremos sospechar que porque se trasladen a otro departamento

no queremos poner las sospechas simplemente en un cambio de nombre eso sí creemos que desde la acción de emakunde aunque se incardine en estos momentos en otra estructura del organigrama

también se impliquen los diferentes departamentos en el diseño ejecución supervisión y evaluación de las políticas que se implementen y por otra parte hemos considerado oportuno

se ha decidido se decidió y sí que lamentamos tengo que decir que no se pudiera tramitar aunque sí se remitió el proyecto de ley

en el calendario legislativo sí estaba previsto la remisión de un proyecto de ley para la erradicación de la violencia contra las mujeres al final se decidió modificar la ley de igualdad vigente del año dos mil cinco

pues hubiera sido mejor haber poder tramitado ese proyecto de ley hubiera sido satisfactorio desde luego

que todavía no se han solucionado en el ámbito de la violencia de género y sobre todo porque creemos que bueno pues era el momento para haberlo tramitado en la legislatura anterior y ese sentido bueno pues ya hicimos la crítica correspondiente

aprovechar para volverles a instar que a la mayor brevedad posible remitan ese proyecto a la cámara el proyecto

que regule la erradicación de la violencia contra las mujeres con un apartado

proponente votará se someten a votación dos iniciativas la del grupo proponente

del partido popular sí que hago un llamamiento a los

con rigor y con como se merece esta enmienda puesto que no creo que esté muy distante de los planteamientos que en este momento

buenas tardes decir que la única realidad que se ha vivido esta mañana en el parlamento vasco es que psoe ha votado junto a bildu y pnv para evitar que se erradiquen los homenajes a eta

y eso es lo que ustedes fomentan con su política de constante victimización

pero luego nos tratan como débiles como inútiles que necesitan que la ley sea parcial para protegernos de la desgracia según ustedes

no no queremos esta ley queremos una ley que nos proteja de hombres y mujeres que nos quieren hacer daño

nos preocupan las víctimas por supuesto las mujeres maltratadas faltaría más pero también los niños ancianos

sabemos que son muchas más las mujeres que sufren esa violencia pero eso no debería convertir al resto de las víctimas en víctimas de segunda hablemos de emakunde emakunde recibe siete millónes de euros al año de los cuales dos millónes doscientos treinta mil son para gastos de personal y otros dos mil millónes en funcionamiento les daré unos datos

euros se gastaron en alojamiento durante el año dos mil diecinueve

treinta y ocho mil ciento noventa y tres euros en traducciones

sin embargo cuáles son los requisitos para poder acceder a la ayuda económica de pago único no cobrar más de seiscientos cuarenta y ocho euros al mes una verdadera miseria la comparación es grave veinticuatro mil euros repito en hoteles

y luego no hay dinero para ayudar a las víctimas para poderlas liberar del yugo de una relación tóxica

ya que con los siete millónes que nos cuesta la institución a los vascos en vez de tener a trescientos personas dedicadas a ayudar a las víctimas de malos tratos

dónde está el resto del dinero seguramente se va por la cañería desde vox creemos que los recursos deben llegar de una manera más ágil a todas las víctimas de violencia sean o no mujeres y usar los recursos en ese sentido evitando crear

no se trata de una petición solo de vox se trata de una exigencia fundamental en la crisis en la que ahora estamos todos inmersos gracias eskerrik asko martínez andrea

y ha sido agricultora toda la vida soy hija nieta

cuñada y sobrina de agricultoras y quiero felicitarles a ellas y a todas las mujeres que trabajan en el mundo rural porque hoy es su día y porque

producen cultivan cuidan de la tierra del ecosistema y de nuestra alimentación y a las que también les afecta el tema que tratamos hoy aquí

y porque el desarrollo del estatuto de la mujer baserritarra no puede quedar ni arrinconado ni en un cajón

tokatzen zen este gobierno podía haber recogido el sentir social

política con los movimientos sociales para transformar los fallos de un sistema que no cuida que enferma y que genera unos niveles de pobreza

ahora en este tiempo necesitamos políticas de igualdad

para enfrentar voces reaccionarias para evitar el aumento de las desigualdades que se derivan de la crisis porque además visibilizan que es el propio sistema

simbólicamente es un gesto que tampoco se entiende sobre todo si se toman como referencias por un lado el premio que recibió en dos mil quince de manos de la onu

se le concedía por haber demostrado la excelencia en la implementación de la ley

y por otro porque en todas las sociedades modernas las políticas de igualdad son troncales con características no solo funcionales

una carta que hizo llegar la comisión consultiva de emakunde a lehendakaritza les decía así desde organismos internacionales en temas de igualdad se insta a los estados

para que el impulso de las políticas de igualdad vaya calando en la sociedad y el mensaje simbólico que conlleva esta decisión

como para todas sus administraciones territoriales y locales es que las políticas de igualdad en este país quedan relegadas a las políticas sociales

debe abordarse desde el ámbito judicial de forma exclusiva o vinculado solamente a políticas asistenciales erabaki horren bidez

alde batera utzita compartimos la preocupación de quienes han expresado su opinión desde que se conoce el cambio de adscripción de emakunde a que con esta decisión

da un paso atrás y vuelve al asistencialismo de hace más de cuarenta años y este tiempo ahora toca dar pasos adelante toca avanzar

una apuesta de su equipo técnico de su equipo político una apuesta clara por supervisar la transversalización de la igualdad en todas las políticas que esté en el eje de la política como corriente principal y que se lleve a cabo de forma efectiva bi eredu nagusi posible zeuden

en realidad lo que aquí estamos planteando y debatiendo es que los recursos técnicos presupuestarios todos los necesarios que se destinen a las políticas de igualdad no sufran ningún retroceso este cambio de adscripción

la no inclusión de la perspectiva de género en todas las políticas

que el margen de mejora además es muy amplio y diría más es que se está haciendo poco pero a tenor de lo que hemos leído en su programa de gobierno presentado el martes estamos preocupadas por mucho que insistan en que la igualdad está transversalizada en todas las políticas de su gobierno no todos los ejes contemplan acciones o iniciativas dirigidas a reducir las desigualdades entre hombres y mujeres

a nosotras sí nos parece que algo ha cambiado porque del repaso de su programa de gobierno y los compromisos relacionados con la igualdad de género vemos

encorsetados en exclusiva en el departamento de igualdad justicia y políticas sociales y los compromisos en torno a erradicar las desigualdades en el resto de departamentos

y les pongo un ejemplo no se entiende que el plan de choque contra la brecha salarial recaiga de forma unilateral en el departamento de igualdad

de empleo donde tan solo se plantea el refuerzo

por ley desde dos mil cinco resulta curioso

cuatro compromisos determinados pero ninguno de ellos es relativo a la transición hacia un nuevo modelo de cuidados igual soy la pesada

pero el modelo de cuidados es que apremia a abordarlo es que es necesario abordarlo gaur eh bilduk aurkeztutako mozioaren alde bozkatuko dugu

sí gracias

señorías hoy vamos a hablar de igualdad de la importancia de las políticas de igualdad del valor de estas políticas de la necesidad de seguir dando impulso a las mismas era importante

y sigue teniendo aún más importancia durante esta porque debemos de salir de la misma sin haber retrocedido en la lucha por avanzar en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres para los socialistas vital hoy esta iniciativa presentada por el grupo eh bildu plantea la disconformidad de haber cambiado la dependencia orgánica de emakunde instituto vasco de la mujer que hasta ahora dependía directamente de lehendakaritza y que ha estado

por haberse integrado en la actual legislatura dentro del departamento de igualdad

y ello porque consideran que dicho cambio puede provocar una degradación de las políticas de igualdad también ha manifestado su preocupación desde movimientos feministas por dicho cambio pero mi grupo parlamentario

estamos convencidos del valor y la importancia que este gobierno vasco da a la necesidad de dar un mayor impulso a las políticas y de poner más medios

y mujeres los socialistas vascos no hubiéramos acordado nunca nada que consideráramos que pudiera ser negativo en la lucha por la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres porque va en nuestro propio su defensa y así se recoge claramente en el acuerdo de gobierno para esta legislatura firmado entre el grupo nacionalista vasco y el grupo socialista

que otorga ser un área departamental desde donde se impulsa para toda la comunidad autónoma

con el apoyo del organismo autónomo emakunde instituto vasco de la mujer dentro de dicho acuerdo se trata de configurar la igualdad como una cuestión central

reforzar el apoyo político y aumentar su visibilidad

los medios necesarios para ello para asumir mayores compromisos y retos desde la transversalidad que tienen las políticas de igualdad y esa transversalidad de las políticas de igualdad

desde un departamento sectorial la creación de ministerios de igualdad es precisamente

europeo o en otras comunidades autónomas en nuestro país vienen realizando bien de forma exclusiva o junto con otras áreas y nosotros hemos seguido la misma senda me sorprende señora gonzález que usted haya hecho hoy aquí

a pensar dos veces que en el gobierno de españa del que ustedes forman parte también hay un ministerio de igualdad específico que encima

entonces me sorprende que haya hecho usted ese discurso porque parece que no tendría por qué existir ese ministerio de igualdad sino que tendría que ser un área que perteneciera

hemos escuchado en su discurso y eso no es así yo creo que no tiene que ser así por otro lado

al lehendakari es claro que emakunde instituto vasco de la mujer organismo autónomo va a seguir ejerciendo las mismas funciones que venía ejerciendo hasta ahora y además

eh bildu se ha indicado que dicho organismo autónomo va a seguir contando con el mismo presupuesto que venía contando no va a tener

su consejo de administración y las funciones de emakunde están

nada va a cambiar va a seguir ejerciendo las mismas funciones

va a seguir liderando la comisión interdepartamental para la igualdad de

las funciones del departamento de igualdad justicia y políticas sociales se determinan en el decreto de estructura que define la composición

este cambio organizativo va a continuar con la centralidad de las políticas de igualdad de nuestra comunidad autónoma incorporando junto a emakunde el departamento de igualdad

en todas las acciones de gobierno y eso es aumentar la apuesta decidida por la igualdad desde el gobierno vasco en ningún caso

lo contrario lo que va a hacer es sumar pero por el carácter transversal de las políticas de igualdad no será el único departamento que va a actuar en esa línea es que ayer en la comisión de trabajo y empleo pudimos escuchar a la vicelehendakari y consejera de trabajo y empleo

al exponer las líneas de actuación de su departamento señaló que entre los ejes de actuación que van el reforzamiento de nuestro sistema de protección social el diseño de todos los planes de empleo y el nuevo modelo del sistema vasco de empleo va a estar la igualdad

con igualdad de oportunidades y derechos pues la igualdad es un compromiso de este gobierno y puso de manifiesto la voluntad del departamento de combatir la discriminación de todo tipo que se puede dar en el acceso al empleo de calidad dado que las desigualdades existentes por diferentes se producen por diferentes razones y criterios e indicó que este gobierno tiene un compromiso inequívoco a favor de esa igualdad plena de las mujeres y su programa de actuación está atravesado en todas sus políticas

y ese compromiso es visión integral también de todo el departamento y dijo por convicción pero también por obligación pues si hablamos de empleo tenemos que hablar del derecho de las mujeres al desarrollo de una vida profesional plena que se les

dignos también dijo que se iba a continuar con el plan especial de la inspección de trabajo contra el fraude en la contratación para garantizar

y perseguir el fraude en términos de temporalidad y parcialidad y a eso hay que sumar también una campaña de inspección específica para eliminar la discriminación laboral

que complementarán con la verificación a través de la inspección

de igualdad y no podía ser de otra forma porque el acuerdo de gobierno se señala

que la igualdad es uno de los ejes de acción de este gobierno y se apuesta por los siguientes compromisos erradicación de la violencia machista y constituir una sociedad libre

y dentro de la misma ya se asume ese compromiso de agilizar la aprobación de la nueva ley de igualdad que regula expresamente la prevención en la lucha contra el fraude pone en marcha una ventanilla única para la atención y protección de víctimas de violencia de género que permitirá la adopción de programas de acción personalizado establece un compromiso contra la brecha salarial otro compromiso

también la lucha contra la discriminación de orientación sexual y cada compromiso recoge medidas concretas yo he dicho unos cuantos

la consejera de igualdad justicia y políticas sociales pidió confianza pero es que el compromiso dentro de este acuerdo de gobierno es firme es claramente firme por eso creo firmemente

en esta legislatura lejos de debilitar la lucha contra la igualdad lo que va a hacer es fortalecerla porque es vital

marcha atrás en algo tan importante porque hablamos de una discriminación que incide sobre la mitad de la población sobre las mujeres

no hemos querido presentar una enmienda a la totalidad porque creemos que lejos de restar como he dicho la estructura

es sumar y agradezco desde luego a la señora etxebarrieta que haya puesto

de la importancia de la lucha por la igualdad al iniciar esta legislatura en este parlamento seguro que vamos a tener ocasiones de poder llegar a acuerdos dentro de la misma estoy segura y eso mismo servirá para avanzar en esta línea irá en beneficio de todos los ciudadanos

y también era baserritarra y mis amamas también eran baserritarras justa y felisa y mis birramamas también eran baserritarras

que este tema nos preocupa y nos ocupa emakundek berdintasun politikak sustatzen dituen

gaur gaurko egun honetan berretsi dezaket orduan esaten nuen acaso no se gestionan y se desarrollan dentro de la presidencia del gobierno vasco las políticas públicas para la igualdad de mujeres y hombres si el propio lehendakari

y a día de hoy con una nueva ubicación de emakunde dentro de otro departamento puedo seguir haciendo la misma afirmación y es que el propio lehendakari urkullu es será

en febrero de dos mil veinte hace solo ocho meses la señora etxebarrieta junto con otras militantes de euskal herria bildu firmaba un artículo de opinión titulado lo que no es sí es no que decía entre otras cuestiones eliminen la labor meramente hacedora de recomendaciones e informes que nunca llegan a ejecutarse de emakunde y creen una consejería de feminismo en presidencia duela zazpi urte

es innegable el importante impulso que en materia de igualdad ha tenido lugar durante todos estos años en nuestro país

que contamos con unos cimientos sólidos bien afianzados que hoy nos permiten estar en un contexto diferente bilakaera baten aurrean gaude estos son los pasos adelante que comentaba la señora gonzález la nueva organización de las políticas de igualdad de mujeres y hombres en el seno del gobierno vasco con un departamento de igualdad justicia y políticas sociales

adscrito al mismo responde a un cambio organizativo del gobierno que en ningún momento supone un cambio en la centralidad que han mantenido las políticas de igualdad en nuestro país este nuevo planteamiento se produce en un contexto marcado por la crisis que afrontamos

afrontar la crisis y maximizar su impacto positivo en la igualdad requiere intensificar la transversalidad y trabajo en común en el seno del gobierno

indartzen da guztietan por estas razones el gobierno ha dado el paso de configurar un departamento con competencias en materia de igualdad y preservar al mismo tiempo la acción de emakunde como organismo autónomo vinculado con lehendakaritza conectando además ambos instrumentos

emakunde sigue manteniendo su autonomía pero se suma a la tarea a un nuevo departamento al que estará vinculado buscando con ello generar la oportunidad de trabajar conjuntamente en cuestiones clave como la conciliación corresponsable

la coeducación o la lucha contra la violencia contra las mujeres estas sinergias ofrecen la oportunidad de luchar contra las situaciones de discriminación múltiple que afrontan las mujeres

aurrean ditugu erronka latzei behar bezala erantzuna emateko ubicar la acción en favor de la igualdad en un departamento no puede suponer

ni mucho menos responder a la voluntad de este ni de cualquier otro gobierno vasco

después de años de esfuerzo y apuesta firme por una sociedad igualitaria en euskadi no tiene sentido son importantísimos los compromisos que este gobierno vasco sigue adquiriendo en materia de políticas de igualdad y no les quepa ninguna duda de que seguirá trabajando en su consecución

la sailburu artolazabal podrá explicar todos sus objetivos en cuanto comparezca comisión badaude koordinadora batzuen edo

partekatu ubicar emakunde en un departamento junto con las áreas de justicia y servicios sociales

es imposible hacer ese tipo de declaraciones conociendo décadas de evolución de la intervención social en euskadi hasta la consolidación de un sistema vasco de servicios sociales universal de responsabilidad pública basado en un modelo comunitario y que reconoce como un derecho subjetivo el acceso a un amplio catálogo de prestaciones y servicios

esta nueva ubicación también está contemplado

en el objetivo estratégico hache uno de beijing entendemos

sí vale brevemente a la señora sánchez sí sí sabemos que hay un ministerio sabemos que

y de hecho si nos pregunta a nosotras pues nosotras seguramente apostaríamos en euskadi por tener una consejería propia

como está en el estado decía

del programa de gobierno nosotras leyendo el programa de gobierno les repito lo que les he dicho antes que no vemos por ejemplo con el tema de la brecha salarial que esté recogido en el apartado de empleo la brecha salarial es que eso sería

puntos que tendría que estar vinculado a empleo lejos de restar es sumar lejos de restar es sumar es para sumar

en los cuatro plenos han salido temas de igualdad no hemos sumado nada creo que no hemos sumado nada y lo mismo si me pongo las gafas de ciudadana creo que a veces restamos

en algo que nos compete y que nos atañe a todos y a todas

restar desde luego pero no por eso vamos a intentar dejar de sumar no por eso vamos a dejar de traer los temas una otra vez porque gai honekin

decía la señora arrizabalaga que ha sido un cambio organizativo no estructural yo es que lo veo al contrario

que organizativo pero bueno lo mismo desde nuestro grupo estamos dispuestas a llegar a acuerdos a

y no me gustaría que se sigan cerrando en banda a cualquier propuesta que venga desde la bancada de la izquierda y de hecho o

encuentro buena disposición pero luego no llegamos a sumar y si no sumamos restamos sobre todo de cara a la ciudadanía eskerrik asko

sí yo he indicado

que desde luego era un compromiso asumido en el acuerdo

que estas políticas de igualdad van a estar en la centralidad de todas las políticas que realice este gobierno vasco y señora etxebarrieta se puede crear un ministerio de igualdad pero puede estar también un ministerio junto con

otras políticas con otros departamentos pero eso no va a impedir nunca

esté donde esté ubicado la coordinación con otros departamentos precisamente por el carácter trasversal implícito a todas estas políticas

de igualdad yo le he hablado antes por ponerle un ejemplo y además es porque han venido

de trabajo y de empleo y decía es que no lo veo bien ubicado con las políticas sociales y de justicia y si estuviera

se junta igualdad no tendría que coordinar también exactamente igual aunque estuviera ubicado ahí con otros departamentos por su carácter transversal y no querría decir eso que solamente se va a ceñir la igualdad al área de empleo

esa transversalidad se va a tener que seguir produciendo siempre porque tiene que ser central

pero toda esa transversalidad se va a tener que seguir realizando entonces no me diga

porque no es así y no se va a hacer así porque no se produce así habitualmente yo además es que ahora recuerdo que por ejemplo que en la novena legislatura me opuse

desapareció la dirección de violencia de género y desapareció la ventanilla única los que estabais también conmigo en esa novena legislatura os acordáis que fui muy machacona porque

no nos gustaba que hubiera desaparecido esa ventanilla única y que era muy positivo para las víctimas etcétera y estoy muy satisfecha de que ahora en este acuerdo de gobierno

creación de esa ventanilla única para favorecer y facilitar esa atención personalizada y unificada a las víctimas de violencia de género y que además era un compromiso que los socialistas llevábamos también dentro de nuestro programa electoral

a las víctimas y eso es por poner un ejemplo de que son cosas que se añaden que se suman y son políticas que desde este departamento

vas a realizar a lo largo de toda esta legislatura y me da igual que esté solo

es realizar todas esas políticas y además coordinarlas

y señora gonzález dice usted en lo referente a la brecha salarial que no entiende por qué está

es que el plan de lucha contra la brecha salarial es interdepartamental y es interdepartamental desde que se creó

aparezca así es que desde el principio si usted se lo lee tiene un carácter interdepartamental evidentemente puede afectar a áreas de trabajo pero es que afecta a otras áreas también del propio gobierno y en ese plan de lucha

todas las actuaciones que tengan que ver con todo lo referente a la brecha salarial entonces no me hable de que está exclusivamente que no entiendo por qué está exclusivamente en empleo porque es que no es así es que ni ha sido así desde el principio ni es así es que afecta a muchos departamentos y todo se encaja dentro de ese plan de lucha de una forma

nosotros estamos abiertos al diálogo y a llegar a acuerdos pero claro

no tengo porqué llegar a un acuerdo per sé para demostrar absolutamente nada es que si no estoy de acuerdo en lo que están diciendo ustedes y que dicen que el cambio que

porque es que no estoy de acuerdo con lo que están diciendo y por eso pues nosotros hemos defendido mantenerla donde hemos considerado que suma

podemosi la señora gonzález habla de buena disposición lo cual le agradezco pero no puede ser que esa buena disposición venga

porque el instituto canario de igualdad ha sido movido de presidencia a la nueva consejería de derechos sociales

gestionada por podemos ustedes aprueban ese cambio me gustaría saberlo porque nos encontramos en la misma tesitura entonces

pero en todos los sentidos señora garrido efectivamente es necesario volver a impulsar la reforma de la ley de igualdad y

estoy convencida eta bukatzeko

sustatuz gobernuaren ekintza guztietan llegarán los acuerdos estoy segura baina bien bitartean ez dago

muchas gracias señora presidenta y buenas tardes de nuevo a sus señorías el punto

viene de una interpelación que nuestro grupo realizó la semana pasada a la consejera responsable del área de justicia aquí presente además muchas gracias

de reforzar y sobre todo de empoderar como se dice ahora a los juzgados porque lo que comentamos el otro día

teníamos sobre el diagnóstico ciertamente a lo mejor alguna opinión discrepante pero lo que sí es cierto es que

tiene siempre una situación de picos además de saturación que es importante disponer de los mecanismos para

a las personas instituciones y empresas porque solamente así se consigue una administración de justicia ágil adecuada para un estado de derecho y sobre todo para que una economía social acabe funcionando

lo digo y lo voy a reiterar lanzamos nuestra tendimos nuestra mano al gobierno y además que apoyan a este gobierno después de ese debate como digo constructivo en mi opinión

presentamos una propuesta de moción que tenía tres puntos fundamentales uno de ellos se refiere al expediente digital que tengamos finalmente un auténtico

se habla también el segundo punto era el relativo al teletrabajo pero incluyendo sobre todo también la posibilidad de realizar juicios telemáticos

de los distintos sistemas electrónicos digitales que existen en españa que ya saben que tenemos unos diez sistemas aproximadamente y que la verdad es que entre ellos existe

de conexión importante los profesionales del derecho que hay en esta cámara lo sabe alguno me lo ha hecho llegar de una forma un poco más o menos privada pero los que se dedican al derecho saben que esto es una asignatura pendiente que tenemos no solamente en euskadi sino en el conjunto

muy atrás en el tiempo a invertir en la digitalización y modernización de los juzgados y luego en el caso nacional se creó un sistema que al final la verdad es que solamente

por eso veíamos que era importante el tercer punto este de la interconexión en resumen y en síntesis señorías para hacer breve este debate esta exposición una digitalización integral porque queremos sinceramente yo creo que el gobierno está de acuerdo en que

cosas fundamentales que en mi opinión un gobierno tiene que hacer y los poderes públicos tienen que facilitar es una estructura administrativa y una administración

ventanilla única y sobre todo que cause menos problemas de los que o mejor dicho que alivie problemas y que no cree nuevos problemas y que sirva para realizar evidentemente todas las transacciones administrativas que sean necesarias bien

original dos cosas que me parecían importantes muy importantes que era un cronograma de implantación

realista con elementos y tal con hitos

bien después de la presentación de esta iniciativa tengo que agradecer además a las responsables de justicia de los dos grupos que apoyan al gobierno laura pérez borinaga y maría jesús san josé la anterior consejera además con competencias por parte del partido socialista de euskadi

hemos coincidido en la necesidad real de acometer esta necesidad que entendemos que es compartida que pueden tener los juzgados euskadi por eso hemos acordado una enmienda de transacción nosotros con los dos grupos que apoyan al gobierno hemos cedido todos evidentemente en las enmiendas es lo que sucede hemos cedido pero hemos conservado los puntos esenciales que entendíamos en nuestro grupo que eran fundamentales no solamente el compromiso ya está en el programa

los compromisos noventa y siete noventa y ocho hablan precisamente de esta cuestión relativa a la digitalización modernización de la justicia

que en la próxima situación que venga un pico procesal porque hay una situación de confinamiento parcial esperemos que no pero dé una restricción de la movilidad se dé una dificultad se dé cualquier cosa si resulta que hay un trabajador que tiene que confinarse en casa

lo estamos viviendo en estos días que tenga facilidad para poder trabajar en definitiva que la próxima situación de

situación delicada que nos pille con los deberes hechos eso es lo que queremos por eso esto es un ejemplo de mano tendida al gobierno que ya dijo además nuestro presidente de grupo en el discurso de investidura del señor lehendakari aquí presente además

vamos a estar ahí con este tipo de propuestas que realmente sean útiles para la sociedad y sobre todo para los juzgados que es algo que pasa desapercibido pero que es fundamental tenerlos bien dotados tenerlos bien dotados para que puedan dar solución a los problemas sociales

teletrabajo juicios telemáticos y sobre todo la

hemos cambiado el tema del cronograma por un compromiso presupuestario y la memoria económica por un compromiso presupuestario

lo antes posible a ser posible consejera yo vamos si quiere usted yo le ayudo pero vamos cuando usted pueda pero lo antes posible y además le digo en serio que le echo un cable si usted quiere

hay dos planes que al final acaban mencionados en la propuesta

hemos sido nosotros generosos en ese sentido y los hemos incluido también

la responsable de uno de los partidos que apoyan el gobierno el plan de justicia digital

particular un poco en términos generales sobre el tema de la aprobación de leyes la aprobación de planes

en las sociedades democráticas avanzadas y en las estructuras políticas y que tiene mucho que ver

y luego eso queda ahí un buen día se anuncia la ley a bombo y platillo o se anuncia el plan y luego se queda

lo cierto es que el gobierno es una cosa complicada estar en el gobierno

pero hay muchas cuestiones que se quedan ahí en el candelero hombre en un país como españa se han llegado hay en este momento vigentes cien mil leyes entre leyes y reglamentos unas cien punto cero aproximadamente

miren en alemania para que nos hagamos una idea más población un país igualmente complejo en cuanto a su estructura territorial hay diez mil comparemos cien mil y diez mil

un poco el ordenamiento jurídico para hacerlo realmente más llevadero

que luego lo tienen que aplicar con los planes puede pasar lo mismo y es que hagamos un plan otro plan hacemos un plan hacemos un acuerdo estupendo sale en la prensa el responsable de prensa de los partidos está contento porque ya salió en la prensa porque tal

por eso nosotros de verdad lo que queremos es que hay que hacerlo y hay que hacerlo ya los planes tienen que tener y esto lo saben ustedes señorías

una consignación de medios económicos que es lo que nos preocupaba y es lo que hemos acordado

y luego muy importante un sistema de indicadores que permita evaluar el cumplimiento efectivo pues

espero y confío de verdad en que estos planes de modernización que se han anunciado de los que nos hablarán y entiendo que la consejera que ha solicitado ya su comparecencia

se traduzcan en las medidas que hemos acordado porque realmente son necesarias

que hay en esta cámara y otros que se han acercado a nosotros últimamente

señora presidenta es garantizar que ciudadanos y empresas y las instituciones tengan un servicio de justicia ágil ágil adecuado eficaz y eficiente que son dos cosas distintas ya se sabe eficacia es conseguir el resultado

para una sociedad democrática avanzada en el estado del bienestar además lo importante es el contenido no es tanto el envoltorio el envoltorio estupendo una ley de acuerdo pero lo importante de verdad señorías es el contenido y lo importante insisto es que en la próxima situación no quiero decir crisis pero en la próxima situación compleja que viva nuestra sociedad de pico procesal técnicamente

es que esta situación nos coja con los deberes hechos y es por eso que hemos acordado esta enmienda y es por eso que la vamos a apoyar y es por eso también que vamos a estar también vigilantes no es un cheque en blanco como todos podemos entender vamos a estar vigilantes pero

para hacer política útil que revierta en el beneficio de la sociedad muchas gracias eskerrik asko

justizia hobetu ahal izateko euskadin y como consideramos además que

establecer plazos por eso establecemos un plazo de seis meses que creemos que es objetivo para cumplir este objetivo que hemos planteado y que

en este sentido también lo recogíamos en el apartado cinco de nuestra enmienda

a que junto a esta estrategia se presente también al parlamento vasco

y detallado de las acciones que llevará a cabo para lograr la mejora de los juzgados y servicios en la administración de justicia en euskadi también de los indicadores de evaluación para medir el impacto de estas mejoras que se lleven a cabo

un listado de mecanismos con los que contará la ciudadanía para llevar a cabo una evaluación continua sobre la implementación de la estrategia y su grado de satisfacción con la misma tres una memoria económica que detalle el presupuesto de estas acciones

un cronograma o esquema temporal realista en el que se detallen las fechas de consecución de hitos fundamentales de esta estrategia eskerrik asko

arabera un juzgado de bilbao del orden contencioso administrativo ez dut emango

es el que más procedimientos tiene pendientes en todo el estado hau da datu objektibo bat eta niri behintzat bai

habla con trabajadores trabajadoras de la administración de justicia para interesarme por este tema

me decía que los despachos de la fiscalía donde ella está destinada son como almacenes de correos

donde se amontonan papel dosieres carpetas

porque en este caso los fiscales pero extensivo también a jueces a letrados y a otros funcionarios de la administración de justicia son incapaces de leer un expediente en pantalla y por qué tienen esta actitud pues seguramente será por falta de herramientas digitales informáticas sí

formación de capacitación también pero creo que va más allá y nos estamos enfrentando realmente a un problema de falta de cultura digital en la administración de justica el reto de la digitalización tal vez no afecta igual a otros sectores que puedan ser más dinámicos o más ágiles pero

endémico y cinco años después de la entrada en vigor de la obligatoriedad de las comunicaciones electrónicas en la administración de justicia

introdujo por reforma de la ley orgánica siete barra dos mil quince cinco años después podemos constatar que esto ha fracasado

todo se hace presencial no se cumplen estas previsiones y es más porque me decían que distintos profesionales y usuarios todavía siguen presentando documentación en papel lo cual lleva a que el personal al servicio de la administración de justicia pierde un montón de tiempo escanearlo estos trabajadores y son palabras suyas porque yo creo que expresan mejor que yo mismo cuál es el problema que viven me dicen que es una aplicación informática absolutamente arcaica todo el sistema informático está obsoleto estamos a la cola con respecto a cualquier otra comunidad autónoma el gobierno vasco va haciendo cortas y pegas

es un horror y me lo dice una persona una trabajadora

algunas palabras a la posición del señor gordillo antes que nada

pero es que también en su moción así lo señalaba oficiales agentes

solicitar la modernización de la justicia invocando unos cuerpos que desaparecieron en la reforma del dos mil tres

por auxiliares tramitadores y gestores judiciales pero en cualquier caso

demasiada preocupación para qué la competencia de justicia se preguntaba cuáles eran los beneficios que generaba

vinculaba la competencia a solapamientos duplicidades sobrecostes

excusatio non petita cuando decía bueno yo solicito procesos informáticos coordinados que no uniformes

que le molesten ciertas competencias que vaya en una dirección de recentralización hoy también parece que le molestaban también

las autonómicas pero como digo es su adn político eta gaur

me gustaría recordar hoy en el décimo aniversario de su fallecimiento a txema fínez

que dio un importante impulso a la modernización de la administración de justicia en euskadi

un cariñoso y afectuoso saludo la pandemia nos ha mostrado muchas cosas cierto

pero a quienes aprovechamos cualquier ocasión para mejorar también nos ha servido para detectar deficiencias en nuestros sistemas y buscar soluciones desde que comenzó la pandemia

el resto de comunidades con competencias transferidas en materia de justicia el consejo general del poder judicial la fiscalía superior del estado

el consejo de la abogacía y dichas reuniones sirvieron no solo para establecer medidas comunes y coordinadas para la lucha contra la pandemia en el ámbito de justicia sino también para conocer las debilidades y fortalezas del resto y las carencias de todos

modernizador que ha tenido la justicia en la pandemia con el gobierno del estado al frente me atrevería a decir que es histórico y tiene tres pilares el real decreto ley dieciséis barra dos mil veinte de veintiocho abril cuya finalidad además de otras más concretas

por la declaración del estado de alarma cuando se produjera el levantamiento de la suspensión y donde se recogía para el tiempo de pandemia y los tres meses siguientes

la prioridad era salvaguardar la salud y por eso se puso distanciamiento citas previas y que no se utilizaran las togas porque van pasando de unos a otros después hubo dos pilares más un real decreto ley once barra dos mil veinte treinta y uno de marzo por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico

en un real decreto que trata sobre economía por lo tanto absolutamente nuevo en el mundo de la justicia

para que una vez que transcurriera y se levantara el estado de alarma el consejo de ministros aprobara planes de reflotamiento o de choque para los ámbitos más sensibles de la justicia social contencioso administrativo señor arzuaga y mercantil con la finalidad de contribuir

todavía hay un tercer pilar más que es una ley la tres barra dos mil veinte dieciocho de septiembre que se aprobó con una amplia mayoría parlamentaria y cuyo objetivo es agilizar

las medidas higiénicas en juzgados y tribunales para evitar el colapso judicial ante la crisis sanitaria estas tres piezas son el mayor elemento dinamizador que ha conocido la justicia en los últimos cuarenta años y ha sido fruto de una comunión de esfuerzo en pro de un objetivo común

la fiscalía superior del estado el consejo general del poder judicial y el resto de operadores jurídicos

eficaz y eficiente y tengo que decir al respecto que la justicia como servicio público no se había valorado lo suficientemente por la ciudadanía ni por el poder político lo que se traducía en un olvido en relación a su actualización y presupuesto

dado su carácter de servicio esencial para consolidar una sociedad justa y democrática un sistema judicial eficaz tiene efectos positivos sobre la economía y la competitividad todas estas reflexiones ya incluidas en el plan bizi berri también han tenido su reflejo en el acuerdo de gobierno de mi partido el partido socialista de euskadi euskadiko ezkerra y el partido nacionalista vasco y dentro del compromiso de un sistema

está el eje de actuación de aprobar un plan estratégico de justicia que establecerá los parámetros para construir una sociedad más ágil

y terminar de implantar la nueva oficina judicial y aquí está el primer punto de su moción señor gordillo

en la configuración de una administración de justicia próxima ágil y moderna como garantía de calidad fomentando la innovación y la digitalización

la digitalización integral de juzgados y tribunales

desarrollo de trámites digitales a través de la sede judicial electrónica y el impulso de actuaciones a través de videoconferencias y se

y finalmente la adopción de un plan de actuación para la reactivación de la actividad judicial para afrontar las consecuencias de la covid diecinueve y aquí está en su punto

que insta al gobierno a que junto con el plan de digitalización presente un listado específico de las acciones memoria económica y cronograma y precisamente esto es de lo que trata un plan

ya le ha dicho lo que va a hacer en este ámbito pendiente de la presentación de las líneas generales y el programa de gobierno

y que se vaya incorporando a las distintas leyes de presupuestos hasta el cumplimiento pleno de todos los compromisos y además está el plan nacional de recuperación transformación y resiliencia

y que se estructura en torno a diez políticas tractoras que van a incidir directamente en aquellos sectores productivos con mayor capacidad de transformación de nuestro tejido económico y social

para que la administración pública actúe como motor de los cambios tecnológicos y entre las reformas que incluye esta línea de trabajo figura la de la modernización del sistema de justicia a esta cuarta política se dedicará

pues bien con todos estos mimbres estoy segura que esta legislatura se dará un impulso a la modernización de la administración de justicia en euskadi lo que redundará en un servicio público para la ciudadanía

debatido en esta cámara y los socialistas sí que queremos avanzar hacia un sistema de gestión procesal común que no único como defendían los populares vascos en aquella ocasión

y con este objetivo ya en el año dos mil once los socialistas aprobamos la ley reguladora del uso de las tecnologías de la información

para definir ya en una norma con rango de ley los requisitos mínimos de interconexión y seguridad necesarios para garantizar esa tramitación electrónica tan necesaria hemos llegado a una enmienda de transacción con populares vascos ciudadanos por lo que les agradezco el esfuerzo para acercar

tanto de quién hace o deja de hacer qué sino de lo que tenemos que proponer conjuntamente para garantizar la satisfacción del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y al mejor cumplimiento de las prestaciones en que consiste el servicio público de la administración de justicia y para conseguir ese fin espero que para esta legislatura tengamos mucho trabajo en común y muchos consensos porque son imprescindibles

sobre la modernización de la justicia porque creo que estamos ante un debate positivo es algo indiscutible todos compartimos la necesidad de seguir avanzando hacia una justicia del siglo veintiuno que no puede ser sino una justicia orientada hacia la persona ágil eficaz y moderna en eso estamos de acuerdo también quiero agradecerle de entrada expresamente su disposición la que ha tenido tanto usted como su grupo para buscar un punto de acuerdo porque fruto de esa voluntad es la transaccional

demostrado el acuerdo es posible cuando se hacen planteamientos realistas sobre cuestiones de profundo calado y de interés público el acuerdo con los grupos que damos apoyo al gobierno es posible

queremos que la justicia sea un servicio público que la sociedad perciba como cercano y resolutivo un servicio en el que la ciudadanía confíe

esa será la mejor contribución que podamos hacer al propio sistema y a quienes precisan de él sabemos que una justicia lenta no es justicia

algo fundamental que es la tutela judicial efectiva partiendo de estas consideraciones

se ha tomado este asunto como prioritario la transformación y modernización del sistema judicial es una prioridad para este departamento

se hizo por quienes en legislaturas anteriores han ocupado esta cartera y también ahora por la sailburu

presentar alguna deficiencia la sociedad saldrá ganando y en esa tarea nos encontrarán siempre necesitamos instituciones modernas

para responder de manera rápida y adecuada a las reclamaciones de las y los ciudadanas y ciudadanos y en la consecución

no partimos de cero tenemos un camino recorrido una senda marcada por la que seguimos transitando euskadi sus instituciones llevan años trabajando en dotar a nuestra administración de justicia de herramientas de modernización de la misma fuimos en su día pioneros en nuestra plataforma de justizia pensando ya en aquel momento en gestionar

no un mero correo electrónico como eran otras plataformas y en esa línea se sigue trabajando y así se ha hecho en estos meses complicados de crisis sanitaria adoptando como ya se ha expuesto

para no paralizar la administración de justicia en la interpelación objeto de esta misma moción la sailburu artolazabal ya expuso las iniciativas que se habían puesto en marcha durante los últimos meses para adaptar el sistema de justicia a las nuevas tecnologías algunas imprescindibles

en el que como también se ha dicho en este foro en el que se debe primar la seguridad y el cuidado de la salud han sido cambios que han llegado para quedarse y han sido inversiones muy productivas lo son ahora

solo por mencionar alguna de ellas el sistema web de cita previa

nuevos equipamientos informáticos para facilitar la celebración de reuniones telemáticas un sistema multimedia de grabación el proyecto telelana la actualización de la plataforma justiziasip podría seguir

nos detalló está claro no se está de brazos cruzados se está trabajando y se va a seguir haciendo porque la justicia también necesita

y no sería ajustado a la realidad decir que nuestro sistema no funciona que está colapsado porque saben que no es cierto mejoras ya se ha dicho que en esas siempre no hay que parar este gobierno es muy consciente y está el cien por ciento comprometido con sus objetivos

de justicia la administración de justicia debe tener un objetivo claro ofrecer atención protección y dar solución a los problemas de las ciudadanas y ciudadanos en ámbitos tan íntimos como el familiar o tan relevantes como el laboral

o penales donde debe primar ofrecer seguridad en el centro del servicio siempre están y estarán las personas tanto los administrados y administradas como el personal adscrito al servicio o como todos los profesionales

precisamente las personas son uno de los cuatro ejes fundamentales de actuación de este gobierno y por eso se está trabajando y existe el firme compromiso de seguir trabajando durante toda la legislatura para consolidar la administración de justicia

y eficaz pero también cercano y eficiente para conseguir una justicia resolutiva y restaurativa porque solo de esta forma

un elemento vertebrador de una sociedad democrática justa plural y desarrollada el propósito el compromiso son

se dotará a la justicia de un marco estratégico para hacer de la ya citada tutela judicial efectiva

para ser más justa más plural y más igualitaria con varios ejes de actuación como se ha mencionado aprobar un plan estratégico de justicia que establecerá los parámetros necesarios para construir esa justicia más ágil y digitalizada centrada en las personas implantar la nueva oficina judicial o ejecutar aquellas actuaciones necesarias para disponer de infraestructuras acordes a la eficiencia energética y la accesibilidad universal pero la justicia no son solo los ciudadanos y ciudadanas que acuden a los juzgados y tribunales

y a otras sedes menores ubicadas en nuestros tres territorios de ellos se ha hablado precisamente también en este momento y por tanto

mediante el desarrollo del cuarto acuerdo de condiciones laborales con objeto de concluir la valoración de puestos de trabajo mantener bajas las tasas de temporalidad y fomentar los planes de formación que parece que son necesarios según algunos

se procederá también a la modernización del instituto vasco de medicina legal un servicio fundamental en materia civil por ejemplo en tramitación de incapacidades

de violencia machista segundo de los objetivos lograr una justicia más ágil más eficaz y digitalizada konpromisoa da

un nuevo plan de justicia digital que ha sido explicado por la señora

con el objetivo de lograr la digitalización integral de juzgados y tribunales y que como nos hemos comprometido con el señor en la enmienda transaccional

con el grupo de partido popular y ciudadanos será remitido a este parlamento y todo ello con la orientación puesta en culminar el expediente judicial electrónico en llevar a cabo el desarrollo de trámites digitales a través de la sede judicial electrónica y el impulso a actuaciones a través de videoconferencia

no debe quedarse solo en las sedes de las capitales en los denominados palacios de justicia porque la justicia debe estar ante todo al servicio del ciudadano y por ello debe ser próxima y ahí entran en liza los

y a los que se dotará igualmente de mayores medios materiales y humanos por último se trata de alcanzar una justicia más próxima reparadora y resolutiva que pivote en las personas y que su fin sea el de dar soluciones con seguridad y con prontitud a los litigios y controversias de ciudadanos y ciudadanas esta finalidad requiere del compromiso

facilitando el acceso a la misma por parte de cualquier ciudadano y agilizando los trámites bien mediante tramitación digital o bien mediante celebración de vistas y otras actuaciones judiciales por videoconferencia para concluir

también en el texto transaccional a fin de lograr llevar a cabo todos y cada uno de estos proyectos de digitalización y modernización

se dotarán las correspondientes consignaciones presupuestarias que permitan alcanzar los objetivos marcados

bertatik voy a ser muy breve desde vox venimos a hacer política constructiva en favor del ciudadano

por todo ello vamos a aprobar la enmienda transaccional porque creemos que desde tiempos inmemorables

en nuestro grupo entendemos que todas las medidas que impliquen modernización y mejoras objetivas para la propia administración de justicia y usuarios deben ser apoyadas

sabemos que la justicia es más justa si se trabaja con unos plazos razonables

por respeto a los grupos que han venido se han preparado el tema lo han leído lo han analizado están aquí y hoy han hecho

y a lo que debe presidir yo creo la actuación en una cámara legislativa como esta pues yo creo que merece la pena contestar brevísimamente bueno en el caso de la enmienda que presentó

esto de que usted ve la palabra empresa o sea la razón por la que no apoya

la moción es porque le asusta que aparezca o desconfía de que aparezca la palabra empresa o por qué porque la administración de justicia no sirve a las empresas las empresas no litigan

ciudadanos empresas instituciones lo cual incluye públicas privadas es decir

iniciativa social vamos yo no lo hice con ninguna intención oscura que parece que me estaba acusando pero bueno

me leí su propuesta me leí su enmienda y bueno vi un par de cosas la verdad es que vi cosas que me gustaron sobre todo la parte que me copia a mí esa me gustó mucho porque dije bueno

pedirle al gobierno que nos traiga aquí una memoria económica y tal además con la misma frase un cronograma realista que luego está repetido

pero claro luego lo que yo me fijé es que lo que hace usted un poco es plantear una concepción distinta o sea

algo distinto y no sé si más ambicioso de lo que yo la planteaba que simplemente es

hay un cierto acuerdo en que es necesario intervenir en esta situación pues correr y lo antes posible presentar una interpelación a la consejera que se ha hecho antes de que la señora consejera haya tenido la oportunidad de presentar su programa entonces yo pensé que para una enmienda

pero para una enmienda del calado que usted proponía señora gorrotxategi yo creo ahí sí que hay que dejarle yo creo que la cortesía parlamentaria

de este parlamento para hablar de este tema pero no ha sido nuestro mejor día pero

invita a que la consejera primero exponga su programa y luego ya una enmienda o una propuesta del calado que usted hace que no tenemos ningún conveniente en discutir no pero bueno yo creo que hay puntos que pueden ser interesantes y que se podrían apoyar el señor arzuaga bueno tiene usted toda la razón

la errata de lo de la antigua nomenclatura

ha sido un poco de formación profesional y costumbre la verdad que la hemos corregido en la transaccional que hoy no aparece

solo se ha referido a la inicial que yo presenté pero vamos la que vamos a votar al final

que yo creo que ahí se recogen parte de las cosas que también proponía no y luego y ya finalmente con esto acabo

y que le molestan competencias y que quiere suprimir leyes vamos a ver el tema del ordenamiento jurídico

la sobrepoblación que puede tener de leyes la gente que se ha dedicado a estudiar esto

el tema es que de lo que se trata es de evitar que existan solapamientos entre normas que existan antinomias innecesarias que exista es de lo que se trata simplemente de eso

porque yo lo que entiendo es que hay que también cuidar el ordenamiento jurídico y facilitar la aplicación su aplicación por parte de los operadores

es una estructura descentralizada en la que predomine una cosa que es una cosa que a veces en

no acabamos de ver es el gran defecto de españa como estado federal incompleto que es el principio de la lealtad federal que es lo que se llama bundes que usted seguramente

para el tema de esta moción yo creo que el espíritu que la anima es

y en el de podemos también se ha dicho muchas veces les gusta citar así frases

también dijo algo parecido dijo es impresionante la de cosas que se pueden conseguir si no nos preocupamos quién se pone la medalla pues oiga tiene usted una oportunidad hoy de votar a favor de esta enmienda

las razones de la enmienda a la totalidad de nuestro grupo parlamentario tiene que ver con varias razones principalmente con que y lo he comentado

que si bien en la digitalización y la modernización de la administración de justicia en euskadi es una asignatura pendiente que debemos abordar

que solamente desde esa perspectiva no se afrontaban los problemas

que tiene el sistema judicial vasco y que merecía la pena introducir

la razón principal por la que presentamos la enmienda a la totalidad que podía haber

a la otra cuestión sinceramente claro que es importante porque en el portal de su intervención de su propuesta

deja ver una concepción del sistema de justicia que choca muchísimo la justicia es

una función del poder público del estado o de quién sea del poder público

que se realiza a través de los servicios de la administración de justicia y que se realiza en favor toda la ciudadanía la ciudadanía empezar a individualizar categorías de ciudadanos en función de usuarios distintos bueno podríamos hacerlo pero entonces tendríamos que hacer un catálogo de

individualizar esas tres columnas como entidades naturales perceptoras de los servicios de justicia

y me preocupaba antes pero ahora estoy un poco más preocupado porque he escuchado a la señora san josé y a la señora pérez y no hay ninguna crítica posible

porque todo funciona bien porque se ha dotado de recursos porque se ha

porque son inversiones más que justificadas porque roza la excelencia porque hemos sido pioneros

consejera y tenía que justificar al propio departamento y al trabajo que hacía y

estamos en una situación de colapso he dado un dato y es objetivo ese juzgado al que me refería de lo contencioso administrativo

un dato objetivo yo creo que no conduce a duda o no permite llevarle la contraria a un objetivo como digo entonces mi problema es autocomplacencia pues no sé a qué va a venir ese plan estratégico por eso digo que

y haremos las críticas que arrancamos ya haciendo y que posteriormente a las soluciones que se le plantee pues también tendremos que hacer y con el señor gordillo sí que hacer un comentario bueno sí que he planteado que creo que parte de un marco mental

sí que creo que tiene una tendencia recentralizadora ha hablado de las prioridades de los letrados que vienen aquí a prestar servicios me imagino que de fuera me preocupo más por los que están aquí por la ciudadanía de aquí por los usuarios por los agentes judiciales

operadores judiciales y sí que me preocupa porque en cierta manera miran mucho al marco español porque también el problema que usted está viendo de la interoperatividad y de la coordinación de los sistemas

incompatibilidad de sistemas y uno de los últimos debates que se dieron en

que son incompatibles con los sistemas digitales informáticos de justicia

problemas y yo precisamente a esos era a los que les prestaba atención en los que espero también que en el plan estratégico que se traiga se le preste solución

nos vamos a decantar por un voto de abstención hacia la posición que ustedes hoy nos traen hasta que leamos ese plan y nos podamos expresar
de una manera pues con más conocimiento de causa eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna

que tenemos una administración de justicia excelente ni que roza la excelencia yo creo

honesta y he dicho que se han detectado carencias

para solucionarlas y con respecto al poder judicial propio vasco

ya conoce la postura de los socialistas con respecto a ello ya tuvimos oportunidad de manifestarla por escrito

para euskadi al grupo elkarrekin podemos ezker anitza le tengo que decir que llega tarde en sus peticiones

o en proceso y otras se han recogido en el acuerdo de gobierno entre mi partido el partido socialista

le voy a poner varios ejemplos se refiere usted a los procesos de mediación en justicia juvenil bien pues

los procesos de mediación cada vez tienen mayor presencia en los juzgados de menores cinco mil ochocientos diez en el período evaluado las mediaciones representan un treinta y uno por ciento

y las mediaciones tuvieron un resultado positivo en el setenta y nueve por ciento de los casos

del departamento de justicia dos mil diecinueve dos mil veintiuno de violencia sobre la mujer que contempla seis ámbitos de intervención y un total de treinta y cuatro actuaciones

interinstitucional formación del personal de los juzgados de violencia sobre la mujer

plan realizado poniendo en el centro a las víctimas escuchándolas y reflexionando con ellas y respecto de sus necesidades

a denunciar y desde luego el miedo a comenzar un camino judicial también se inició un plan estratégico de justicia que tengo que decirle que el plazo que ha dado de seis meses la verdad un plan estratégico requiere

porque si tenemos que hablar con todos los operadores jurídicos tenemos que hablar con todas las administraciones y tenemos que hacerlo bien desde luego se necesita mayor tiempo y en nuestra comunidad autónoma desde luego somos pioneros en instaurar la justicia restaurativa con lo cual bueno tras diez años de servicio y mediación intrajudicial

en los países más avanzados de europa en justicia restaurativa es un servicio inédito este momento y ya lo tenemos implantado aquí en euskadi

y bueno yo creo que en principio me reafirmo

principalmente las cuestiones los objetivos los planteamientos que la sailburu artolazabal el otro día presentó en la interpelación que le realizó

martínez que haya apoyado esta enmienda eskerrik asko eskerrik asko san josé

excelencia bien al contrario las palabras que he utilizado

deficiencia y mejora continua y sigo reiterando en esa tarea

así mismo he utilizado esta sí que he utilizado la palabra pioneros

es que es una realidad que fuimos pioneros la administración de justicia vasca fue pionera en implantar la primera plataforma que trataba relativa a la gestión del expediente

en su enmienda habla también de establecer instrumentos para resolver la saturación provocada en la crisis durante la crisis sanitaria

efectivamente también se trata o se pretende adoptar un plan de actuación para la reactivación de la actividad judicial para afrontar las consecuencias de la covid hemeretzi y también recoge el derecho a expresarse en euskera

efectivamente así mismo también dentro del objetivo de justicia cercana dirigida a las personas se pretende avanzar en el plan de normalización lingüística para hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a la utilización del euskera también en el ámbito de la justicia

la verdad es que con respecto de su enmienda no sé muy bien por dónde coger el texto de su enmienda

juzgados de violencia por un lado de servicio de mediación por otro de justicia gratuita la realidad es que todos ellos son temas de profundo calado y de un importante interés social por eso

iniciativas sobre dichos temas que seguro que van a dar lugar a un debate muy positivo igual que ha sido el que actualmente

aunque ya le adelanto que también todas ellas son materias sobre las que este gobierno está trabajando

en ese objetivo de una justicia dirigida hacia las personas

de violencia machista desarrollando un plan de víctimas de violencia sobre la mujer reforzando pretendiendo reforzar la actuación de las unidades de valoración forense integral y de los equipos psicosociales pretendiendo también

a esas víctimas incidiendo en la coordinación institucional en la formación del personal de los juzgados de violencia sobre la mujer en la adecuación de las instalaciones y en conseguir el refuerzo de los servicios de información

a las víctimas el plan zurekin pero también dentro del objetivo y el propósito de que la justicia sea ante todo efectiva

medios alternativos de resolución de conflictos fomentando la mediación judicial o consolidando la justicia restaurativa en los órdenes penal y familiar fomentando prácticas de negociación y mediación intrajudicial en otros órdenes como el contencioso administrativo social o civil

una estrategia vasca para la mejora de la justicia y sinceramente me ha aparecido un totum revolutum en el que tan pronto hacen referencia

de la estructura de los juzgados y los servicios de atención a la víctima que vincula a entidades de reconocida experiencia en defensa de derechos humanos

por fin de modernización y digitalización de los juzgados planteando que se ejecute en equilibrio con la protección de los derechos de grupos de especial vulnerabilidad o con las personas que sufren problemas de salud

tiene un compromiso claro lograr una administración de justicia moderna digitalizada y en ella